hain zuzen ere en araba bizkaia y gipuzkoa hoy en día existen cien mil desempleados y desempleadas que no perciben ninguna prestación del estado por otra parte

que perciben la rgi unas cincuenta mil están en activo por lo tanto de qué están viviendo o mal viviendo

fuera del sistema esta pregunta también se la hicimos al señor consejero en la interpelación

qué podemos hacer entre todos y todas para que este numeroso grupo de personas

el parlamento nos insta a tomar medidas para fortalecer nuestro sistema de protección social nondik aterako dugu dirua

por otra parte antes de ayer mismo analizamos los últimos datos del desempleo

que son buenos pero de la misma manera también señalamos que hay que tomarlos con cautela y que no podemos caer en la autocomplacencia que tantas veces aquí citamos porque no es bueno hacer una lectura sesgada de los datos entre otras cosas porque no podemos obviar que estamos

argi dago ez dela momentu egokiena autokonplazentziaz hitz egiteko y cómo es posible que habiendo menos desempleo aumente la brecha social y el número de personas en situación de pobreza no descienda

qué tipo de empleo se está creando qué tipos de contratos se están tramitando si hablamos de empleos con contratos semanales si hablamos de salarios miserables

si tenemos en cuenta que el noventa y cinco por ciento de los casos los contratos que se llevan a cabo son temporales

que durante dos años intentan reinsertarse laboralmente no lo consiguen ahora entendemos por qué aún descendiendo el número de desempleados y desempleadas la tesitura de las personas que se encuentran en situación de exclusión social de pobreza o de pobreza extrema

que pretenden desarrollar un acuerdo previo firmado entre varios grupos de esta cámara con el ánimo de mejorar la situación de miles de vascos y vascas

para que las prestaciones económicas lleguen a las personas que de verdad lo necesitan ustedes siguen afirmando que hay personas que no lo necesitan de verdad se lo dije a su compañero de grupo para nosotras y para nosotros hay personas

y punto no creemos que hay gente que lo necesita o que no y que haya que hacer distinciones

el grupo socialista nos ha presentado una propuesta demasiado general a nuestro entender

eh bildu con esta propuesta pretende contextualizar y concretar aunque es posible que en algunos aspectos que ustedes plantean coincidamos y que en un futuro

y lo mismo digo al resto de grupos eh bilduren ustez aurrerapauso zehatzak eta sendoak emateko momentua heldu da

lehendakari consejero en el contexto económico actual cualquier impulso que permita paliar el drama del desempleo ha de ser recibido de manera positiva en esta cámara el último dato del desempleo en euskadi del mes de mayo

sin embargo cuando centramos el detalle en la calidad del empleo creado vemos que sigue habiendo indicadores preocupantes

con una temporalidad realmente preocupante el setenta por ciento del empleo creado corresponde al sector servicios sector con gran volatilidad paralelamente

de los contratos firmados tan solo el seis por ciento ha sido de carácter indefinido en euskadi en mayo se han firmado un uno por ciento menos de contratos indefinidos y el dieciséis coma seis por ciento más de contratos

a las personas que encuentran un empleo atender sus necesidades básicas estos datos son preocupantes y los socialistas nos negamos a que esta situación venga para quedarse es necesario crear empleo empleo digno

y cubrir sus necesidades básicas sin necesidad de que tengan que acudir al sistema de protección social obligado es referencia el informe presentado ayer mismo por cáritas euskadi

cáritas no percibe que la mejoría económica que tanto se anuncia

que atienden en sus servicios afirman que la pobreza y la vulnerabilidad social siguen creciendo

que han encontrado un puesto de trabajo hecho que viene sustentado por los datos que ofrece lanbide servicio vasco de empleo que indican que el dieciocho por ciento de las personas

para complementar sus ingresos laborales y poder pagar sus gastos básicos y esto también es muy preocupante asimismo advierten desde cáritas que el treinta y uno por ciento de las personas atendidas en el dos mil catorce llevan más de cinco años recibiendo sus ayudas

lo que les lleva a concluir que la situación de pobreza en euskadi persiste y se está cronificando

vasco constituye en este momento para miles de personas y familias la última garantía para atender sus necesidades más básicas

sin embargo no debemos conformarnos tan solo con ofrecer una protección social las políticas públicas

y conseguir la generación de empleo digno y de calidad tenemos que hablar de las generaciones hipotecadas en esta crisis de las personas jóvenes

de generaciones excluidas del sistema mayores de cuarenta y cinco mayores de cincuenta y cinco que llevan más de tres años en paro y que sienten que no tienen oportunidad en el mercado de trabajo

la base de la recuperación económica está en las políticas públicas que incentiven el empleo digno y de calidad

en la educación en las pensiones enla protección social en la redistribución de la riqueza en reducir la brecha de desigualdad en las políticas fiscales más justas y equitativas

hablan por sí solos para darnos cuenta que un gobierno no puede limitarse a ser notario y relatar lo que está pasando en la calle en los medios de comunicación día sí y día también por encima de los datos de los porcentajes están las personas que ni llegan a cubrir sus necesidades básicas en desempleo y que no encuentran trabajo y que cada día son más y esto requiere de un gobierno vasco que adopte medidas urgentes para enfrentar el paro y la pobreza

en riesgo de exclusión severa requieren un mayor esfuerzo por parte del ejecutivo vasco

relativa a un plan especial contra la pobreza y exclusión social en la que instábamos al gobierno vasco a que colaborasen con las diputaciones forales y ayuntamientos

un plan especial contra la pobreza y la exclusión social para aquellos municipios y comarcas que por circunstancias especiales

las medidas necesarias para favorecer la inserción socio laboral

y estrategias conjuntas de carácter interinstitucional que permitan coordinar las intervenciones de los diferentes agentes a partir de objetos enfoques e

y pedíamos al gobierno vasco que tomase decisiones decisiones estructurales que atajen las causas del problema y decisiones urgentes que surtan efectos

con un amplio acuerdo social decisiones que incentiven el empleo y la protección social hace

se celebraba en este parlamento el pleno monográfico sobre la estrategia integral a desarrollar

los socialistas presentábamos veintitrés propuestas de resolución para paliar el paro y la pobreza las situaciones de necesidad que están pasando miles de personas

están en el desempleo y no encuentran trabajo o que teniendo trabajo su salario no es garantía suficiente para vivir con dignidad hoy volvemos a debatir sobre la pobreza y la exclusión social sobre las personas desempleadas y el sistema de protección social vasco eh bildu

cinco puntos referenciados a la ley dieciocho barra dos mil ocho de la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social

y plantea modificaciones de dos artículos concretos pero el problema va mucho más allá el partido popular por su parte

en el discurso de que las ayudas lleguen a quien realmente lo necesite parecen no entender que aquellas personas

porque no llegan a fin de mes que es el desempleo y la precariedad laboral

en mayor medida y han sido precisamente las políticas de recorte del partido popular las que nos han traído hasta aquí

apuesta por mantener y mejorar y eso está bien pero ustedes dicen en la medida de lo posible en la medida de lo posible el sistema de protección social vigente como ejemplo de solidaridad y de lucha contra la pobreza y la exclusión social pero no concretan

referentes a qué es la medida de lo posible la enmienda del grupo socialista recoge propuestas que ya han sido aprobadas en este parlamento y apoyadas por los grupos parlamentarios de la cámara

para evitar la cronicidad de la pobreza y conseguir la generación de empleo y de calidad porque ahí está la base del problema los socialistas vamos a mantener nuestra enmienda a la totalidad al considerar que las propuestas del resto de grupos obvian hablar en sus enmiendas y abordar el principal problema el desempleo y la precariedad laboral que es la que conduce a las personas

los socialistas apostamos por un sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social sólido que limite las situaciones de pobreza y exclusión social

que favorezca el tránsito al empleo y que garantice la dignidad de aquellas personas

o que sean perceptoras de una pensión no obtengan los ingresos mínimos que se determinen

necesaria y mejorable la integración de los sistemas de garantía de ingresos e inclusión social con las políticas activas de empleo

una mejora en la gestión tanto en los recursos humanos como los materiales de lanbide los socialistas en nuestra enmienda pedimos en el primer punto que el parlamento vasco se comprometa a perfeccionar para fortalecer el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social

de ingresos la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencias social a quien pretende recortarlos el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que teniendo en cuenta las especiales dificultades por las que pasan muchas familias para cubrir todas sus necesidades básicas personas que viven en situación de pobreza y exclusión social así como quienes se están quedando sin ningún tipo de prestación por desempleo

a fin de integrar el mismo a quienes hoy están excluidos arbitrando las medidas necesarias para atender sus necesidades

proponiendo para ello incluso las modificaciones reglamentarias que fueran necesarias

que permita a los ciudadanos atender con suficiencia todas sus necesidades en este sentido insta al gobierno de españa a derogar la reforma laboral que solo facilita los despidos

y además que deja a miles de trabajadores a expensas de la voluntad de su empleador favorece la contratación inestable permite el recorte discrecional de los salarios

que necesitan acudir a las ayudas públicas para completar sus escasos ingresos

salariales dignas incluyendo a aquellas referidas a la igualdad de hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral

a que presente en la cámara a la mayor brevedad posible el informe comprometido en noviembre de dos mil catorce sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia salarial que saque a la luz situaciones aun ocultas sobre la pobreza laboral

y a establecer una política integral de lucha contra la pobreza en el ámbito familiar así mismo a mejorar y a agilizar el funcionamiento de lanbide y a remitir a la cámara la evaluación y resultados de las acciones llevadas acabo

argi eta garbi zein den gastatzen den diru kopurua efectivamente según las noticias de los datos del desempleo hay más de cinco mil personas menos en las listas de desempleo en las listas

y ello nos lleva a tener también que tener muy en cuenta que mientras siga habiendo personas en las listas de desempleo y también

hay que seguir tomando medidas que consoliden la recuperación económica y medidas destinadas a reducir la tasa desempleo el sistema de protección de euskadi es uno de los sistemas más avanzados más solidarios no solo del resto de españa sino del resto de europa

más vulnerables y eso además se refleja claramente

en los presupuestos destinado a cubrir las prestaciones económicas previstas en la ley para la garantía de ingresos y social hablamos de cuatrocientos sesenta y uno millónes de euros de dinero la cantidad consignada

que si bien las paga el gobierno vasco son gestionadas directamente por los ayuntamientos en ese sentido euskadi representa el cuarenta por ciento de las rentas mínimas

autónomas nosotros a lo largo de esta legislatura

pero especialmente en esta legislatura hemos planteado debates en esta cámara con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema

decía la señora blanco que hemos presentado una enmienda muy general bueno yo creo que es lo que procedía a la iniciativa que ustedes han presentado para

que como decía no es la primera vez que plantean reivindicaciones en el sentido propuesto pero como decía

hecho una enmienda de carácter general es lo que procedía y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una en tramitación una iniciativa legislativa popular que plantea también cambios para mejorar el sistema de protección en euskadi que se está tramitando ya en esta cámara como decía los déficit desde el funcionamiento del sistema están ahí y para nosotros el sistema es manifiestamente mejorable

yo creo que se ha visto de forma clara que hay aspectos de mejora claros en la tramitación de los propios expedientes de la prestación complementaria de vivienda y la rgi

claros en el funcionamiento del propio lanbide en la gestión de estas prestaciones como decía y eso lo corrobora el dato de los cobros indebidos o

de lanbide servicio vasco de empleo cuya cantidad en respuesta parlamentaria se ha cifrado en ochenta y seis coma siete millónes de euros de la que no se ha recuperado aproximadamente

existen también situaciones abusivas y de fraude que están ahí y todos conocemos noticias que además se publican en los medios de comunicación y que también se ha cifrado en veinte coma nueve millónes

situaciones abusivas de fraude pero con el objeto de que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan porque en el sistema tienen que estar las personas que realmente lo necesitan

y no cumplen los requisitos o que han cambiado sus circunstancias y ya no tienen que estar en el sistema

que lo necesitan para salir de su situación de necesidad y de vulnerabilidad por lo tanto consideramos que es necesario

por otra parte también hemos denunciado y hemos criticado que lanbide servicio vasco de empleo el fin de la empleabilidad la necesidad de vincular el sistema a la empleabilidad la activación del empleo de las personas perceptoras de ayudas sociales

que tiene encomendados también lanbide de acuerdo a la legislación vigente la tasa de intermediación es muy baja hace ya un al principio de la legislatura se nos daba la cifra que estaba en un dos coma uno por ciento recientemente en una respuesta parlamentaria

baja en relación a los objetivos marcados y en ese sentido sí que quiero señalar el objetivo el compromiso del gobierno vasco en relación a una resolución aprobada

está muy lejos de cumplirse ese objetivo por lo tanto creemos que hay que corregir el rumbo para obtener resultados resultados efectivos y que el objetivo de las personas perceptoras de ayudas sociales sea su inclusión laboral su reinserción laboral y desde luego la empleabilidad y en ese el sentido el sistema hace claramente aguas y que luego

lanbide sea eficiente y cumpla como decía anteriormente sus objetivos me voy a referir a las enmiendas presentadas

inicial creemos que no es ni realista es una iniciativa absolutamente demagógica

que conllevarían muchas de las medidas propuestas lo que conlleva que la iniciativa adolece de una falta de rigor clara

se va a sustanciar en un futuro próximo en esta cámara y en relación a la enmienda del partido socialista tengo que decir que bueno son generalidades que se podrían pero que falta algo de concreción en el sentido de más exigencia al gobierno vasco en relación sobre todo a los déficits y deficiencias detectadas y luego desde luego

que es en el asunto de la reforma laboral como se puede imaginar el partido socialista

apuesta por mantener y mejorar en la medida de lo posible el sistema de protección social vigente ejemplo de solidaridad y lucha contra la pobreza y la exclusión social es algo con lo que podemos estar de acuerdo pero sin duda también se puede quedar corto porque además dicen en la medida de lo posible cuando está claro que a tenor de los datos a tenor ya de los debates que ha habido en esta cámara

hay ámbitos de mejora en los que hay que arbitrar y poner en marcha acciones concretas

una enmienda pero creo que recoge en esencia las posiciones del partido popular y los puntos que consideramos absolutamente imprescindibles en relación a la defensa del sistema de protección con una mejora de esta sistema así como el funcionamiento de lanbide

y se cumpla la empleabilidad de los perceptores de ayudas sociales en principio nosotros mantendremos nuestra enmienda

dieciocho meses consecutivos con una tendencia cada vez mayor a ampliar la distancia con la situación del mismo mes del año anterior además el registro en la seguridad social ha experimentado un incremento de cuatro mil quinientos noventa y tres nuevas afiliaciones y los contratos crecen ya al ritmo anterior a la crisis por lo tanto queda claro que las medidas y planes puestos en marcha por el gobierno vasco están dando

al inicio de la legislatura el lehendakari anunció

muy duros en cuanto a la situación del empleo y la reactivación económica y que después empezaría a mejorar poco a poco y así está siendo a pesar de que la oposición se ha cansado de decir que el gobierno vasco estaba paralizado

los datos demuestran lo contrario el gobierno sembró puso los mimbres y condiciones para generar empleo y ahora se están recogiendo los frutos y esperemos poder seguir recogiendo hasta que la cosecha sea excepcional beraz apurka apurka

mencionó el acuerdo transaccional alcanzado sobre la adecuación del decreto regulador de las aes al que usted hoy también ha hecho mención

y nuevas situaciones de pobreza no cubiertas pues el gobierno

incluyendo varios aspectos novedosos que todavía no ha sido tratado en el órgano interinstitucional de servicios sociales porque debido a las elecciones eudel entendía que era mejor esperar a la constitución de los nuevos ayuntamientos y diputaciones

al respecto pero sí que les voy a adelantar algunas de las cosas que dicho borrador incluye algunas de las medidas cuestiones relacionadas con la pobreza energética cuestión sobre la que hemos debatido en múltiples ocasiones en este parlamento posibilidad también de habilitar las mancomunidades para el abono de las ayudas

que se consideren una emergencia por parte de los ayuntamientos poniendo en valor el mejor conocimiento que tienen los propios

y también se incluyen medidas para responder a la problemática hipotecaria toña sailburuak azaldu zuen bezala jaurlaritza

ari dira apurka apurka eta etorkizuna itxaropenez ikustea egiten digutenak por lo tanto teniendo el sistema de protección social que tenemos que se está adecuando además para dar respuesta a realidades no previstas en el tema del decreto

que están dando resultados objetivos y positivos no apoyaremos la iniciativa de bildu

que no vemos la necesidad de realizar un estudio técnico ya existen estudios en los que el gobierno se ha basado y además a los que se hizo mención en aquel debate de marzo

entendemos que pretende abarcar todas y cada una de las posturas de iniciativas

como por ejemplo un rechazo a la reforma laboral del gobierno de rajoy que ya hemos rechazado de forma contundente en varias y múltiples ocasiones

más del ámbito de la exposición de motivos tratando de justificar el porqué de lo que se solicita lo que ha dificultado el poder entrar a negociar máxime cuando la iniciativa

hay otra serie de cuestiones que no podemos aceptar porque habla por ejemplo de modificación del reglamento para dar cabida a supuestos distintos a los contemplados en la ley lo cual es

por eso tampoco apoyaremos la enmienda a la totalidad del partido socialista

hemos estado cerca de poder alcanzar una transacción aunque al final no ha sido posible y pensábamos abstenernos su enmienda a la totalidad porque estamos de acuerdo con lo que solicitan ya que el gobierno viene trabajando en la mejora de lanbide desde que adquirió las responsabilidades de gobierno y también

a fin de que ninguna de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley queden fuera del sistema pero oído su discurso señora garrido de mezclar una vez más fraude con ayudas vamos a votar en contra de la misma eta bakarrik gurea

buenos días gracias presidenta se debate una iniciativa

un día después de que cáritas haya presentado un informe en concreto su memoria de dos mil catorce que vuelve a evidenciar lo que ya sabemos y que

hay miles de personas que están sufriendo que están padeciendo la crisis económica la pobreza la precariedad laboral y la exclusión social

que euskadi tiene un buen sistema de protección social del cual pues todos nos sentimos

pero esto no es óbice para que se puedan plantear determinadas medidas para mejorar ese sistema y atender a miles de ciudadanos que a día de hoy quedan

la respuesta que merecen por parte de las diferentes instituciones a nosotros nos parecen correctas en general las propuestas que

del grupo que ha presentado esta iniciativa antes o después de un modo u otro son asuntos que nosotros hemos defendido en esta cámara al menos

y eh bildu lo que propone es realizar un estudio técnico sobre los requisitos para ejercitar los derechos recogidos en la ley de garantía de ingresos con el fin de garantizar el acceso a numerosas personas que actualmente tienen necesidades y quedan fuera de la percepción de dichos derechos esto

también se propone diseñar una campaña para dar a conocer y prestigiar los derechos recogidos en la

y se propone también diseñar una hoja de ruta para extender a los jóvenes mayores de dieciocho años que se encuentran en paro los derechos recogidos

y a realizar una serie de modificaciones legales que están ahí claramente expuestas que lo que pretenderían sería

determinados recortes que se han impulsado en los últimos años en dicha ley recortes que nosotros mismos cuando se llevaron a cabo los denunciamos y que en ningún caso apoyamos y finalmente se propone incrementar en un diez por ciento las ayudas de la renta de garantía de ingresos y a eliminar el límite económico de doscientos cincuenta euros en la prestación complementaria de vivienda con el fin de superar los recortes puestos en vigor y mantenidos y en la prestación complementaria de vivienda en general podemos compartir las propuestas que se plantean por parte del grupo proponente quizás la

más dudas nos suscita pero en general y en relación a las demás las compartimos las hemos venido defendiendo y en relación a los recortes que ahí se denuncian

en contra de esos recortes cuando se llevaron a cabo por esta cámara sin embargo no hay consenso suficiente

no es que no haya consenso es que no hay apoyo suficiente se pueden traer estas iniciativas y estas propuestas tantas veces como sean necesarias pero hay un bloque amplio en esta cámara que reiteradamente va a votar en contra de estas propuestas de hecho algunos de los recortes que en esta

pues fueron acordados por el partido socialista de euskadi y el partido popular la pasada legislatura

hoy día los apoya con lo cual en fin digamos que hay mucho que decir en relación a esta cuestión es un debate que a día de hoy teniendo en cuenta las mayorías y las minorías de esta cámara pues es un debate perdido que no tiene oportunidad de salir adelante dicho esto

que no se fijen tanto en los pocos logros obtenidos por cierto muchos de ellos

mérito de este gobierno sino consecuencia de determinados datos internacionales consecuencia de datos que no son

por este gobierno que no se fijen ustedes tanto en los pocos logros obtenidos especialmente el gobierno sino que sobre todo se fijen en lo mucho que queda por hacer

no en decir que se ha incrementado la afiliación un determinado porcentaje claramente insuficiente o que el desempleo se ha visto reducido en unas cifras mínimas

principalmente es la realidad en la que se encuentran miles de ciudadanos vascos víctimas de la situación económica de la pobreza de la exclusión social o de empleos que son claramente precarios en eso se debería fijar este gobierno de eso debería hablar también el grupo que apoya al gobierno

no creo que la situación sea como para sentirse orgulloso este gobierno en relación a esta cuestión

en los miles de ciudadanos vascos víctimas de la pobreza de la pobreza infantil de la pobreza energética de la precariedad laboral y de tantas situaciones que nosotros hemos venido denunciando

nosotros no hemos presentado enmienda pero finalmente vamos a votar la enmienda del grupo socialista compartimos en general todo lo que se plantea en esa enmienda creo que es una enmienda muy completa quizás excesivamente genérica o inconcreta

todo lo que debería hacerse y además son cuestiones sobre las que ya nos hemos posicionado en este parlamento

ha apoyado en el pasado en concreto perfeccionar para fortalecer el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social en concreto desarrollar y completar

excluidos también la propuesta para instar al gobierno a derogar la reforma laboral una reforma laboral que ha provocado la precarización del empleo y el surgimiento de una nueva clase social

o iniciativas como presentar en la cámara a la mayor brevedad el informe comprometido en noviembre de dos mil catorce sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia salarial creo que son medidas que deberían salir adelante y que nosotros

vamos a apoyar también se insta al gobierno a establecer una política integral de lucha contra la pobreza ahí están los datos reflejados no solamente en el estudio hecho público ayer

la pobreza que existe la pobreza infantil la pobreza energética en fin situaciones dramáticas que las sufren miles de ciudadanos vascos y también proponemos

para una tramitación más eficaz de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda y para que lanbide definitivamente útil también para crear empleo digno y de calidad y que cumpla su función principal que es la de la empleabilidad y la inclusión laboral para miles de ciudadanos vascos que están en situación de desempleo por lo tanto en fin vamos a apoyar la enmienda

nos parece que es la más completa y la que está también en mejor disposición de que esta cámara la apruebe por eso

hay que seguir instando al gobierno a tomar cartas en el asunto

miles de ciudadanos vascos no en esos pequeños datos positivos sino en lo mal que lo están pasando miles de ciudadanos vascos a día de hoy creo que el gobierno vasco se ha mostrado no solamente

a todas estas situaciones y por lo tanto nuestra misión como grupo de la oposición es dirigir las miradas

para exigirle mucho más de lo que ha hecho hasta ahora nosotros vamos a abstenernos en relación a la propuesta original y vamos a votar a favor de la enmienda del grupo socialista

bai eskerrik asko berriro voy a empezar contestándole a la señora garrido cuando usted dice que esta ilp vendrá para mejorar el sistema permítame que le diga que espero que sea

minoritaria de esta cámara por lo menos nosotros no compartimos ese planteamiento dice usted que las personas que lo necesitan deben acudir al sistema no los que no cumplen los requisitos oiga los requisitos están regulados en la propia ley están regulados en la propia ley ahí se recoge

tiene que recibir esos derechos y quién no se recoge en la ley de garantía de ingresos e inclusión social por lo tanto me gustaría que nos aclarase en el segundo turno

creo que lo que ustedes plantean son cosas diferentes porque nosotras y nosotros con esta propuesta lo que intentamos es dar una salida entre otras cosas a esas personas que se nos quedan fuera del sistema ahora mismo en cambio ustedes lo que pretenden hacer es

lo contrario por eso hoy creo que estábamos en dos polos absolutamente opuestos arregui andrea bai langabezia jaitsi da esan dugu eta berri ona da

o sea no con que baje el desempleo es suficiente baja el desempleo pero es que tenemos ahí un grupo de personas y unas familias que no salen de esa situación entonces pues nos parece que una propuesta una enmienda general en este momento

hay que traer propuestas nuevas veremos ese decreto no lo hemos visto cuando lo veamos si tienen a bien

aquella proposición no de ley pues lo podremos valorar y dice usted que la gente ya conoce cuáles son los derechos sociales que existen permítame que lo dudemos

también para que accedan sin estigmatizaciones

tirar de sus amigos antes de acudir al servicio social de base

porque simplemente les da apuro acudir al servicio social de base

en gipuzkoa de manera positiva y propositiva

y dos semanas después olvidarse de todo no entendemos por qué cuando se presenta una ocasión como esta como la que hemos traído aquí que hemos admitido que

mejorar se podrían quitar puntos se podrían añadir pero cuando se presenta una ocasión como esta

se vuelven a quedar ustedes en generalidades sin concretar nada nada nuevo igual que antes y repetimos ante situaciones nuevas medidas

salgan nunca de la situación en la que se encuentran la apuesta de hace dos semanas por lo tanto etérea etérea propaganda o falta de valentía ustedes sabrán como también sabrán supongo que volveremos a traer de nuevo

por supuesto hasta que consigamos el apoyo mayoritario y traeremos además propuestas concretas basadas en la justicia social

porque la lucha por los derechos sociales y la justicia social forman parte de nuestra propia personalidad e ideología política y porque los pasos que demos serán siempre siempre para avanzar en este sentido para avanzar en derechos sociales y no para retroceder señor toña y le hubiera dicho señor urkullu también si hubiera estado en el escaño

uno de los retos más importantes que tenemos que abordar

saben que nuestra propuesta es asumible y también saben que su respuesta en este caso es insuficiente eskerrik asko

nada simplemente para dar las gracias a los grupos que van a apoyar la enmienda presentada por el grupo socialistas y decir que a nosotros sí que nos preocupan las personas que se encuentran en desempleo y que quieren trabajar que quieren encontrar un empleo digno y de calidad y también las familias

permiso desde el escaño me decía la portavoz de

que aquellos que cumplen los requisitos a qué me refería pues obviamente efectivamente hay unos requisitos estipulados la pasada legislatura se modificaron

socialista y el partido popular son los que ustedes hoy plantean modificar que ya lo han hecho en otras ocasiones nosotros pensábamos que esa modificación suscrita en ese pacto y plasmada en ese pacto

el sistema y desde luego para garantizar también la sostenibilidad del sistema hacerlo más justo y más solidario desde luego estamos en posiciones radicalmente en contra

que cumplirlos y los que estén en el sistema tendrán también que seguir cumpliendo esos requisitos mientras sigan recibiendo las prestaciones por eso también

se modificaban los plazos de revisión de esos requisitos para efectivamente

y no se comunicaban por lo tanto yo creo nuestro mensaje es muy claro yo creo que una mayoría de ciudadanos vascos lo apoyan que es que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan yo creo

que hace que el sistema sea efectivamente justo solidario que es lo que tiene que ser y luego yo creo que otra parte y otra pata de nuestro discurso es que

del sistema sea la empleabilidad que las personas que están en el sistema tengan una oportunidad de acceder al mercado laboral y es donde entra lanbide y nosotros hemos cuestionado el funcionamiento de lanbide no solo en la gestión de estas prestaciones sino también en el cumplimiento de este fin

el partido nacionalista vasco no las quiera ver pero ahí están y ustedes

apunto de haber suscrito haber llegado a un acuerdo con el partido popular y a eso se refería la enmienda del partido popular no solo a eso evidentemente pero que hay situaciones que hay que subsanar que hay que mejorar que hay que atajar y las situaciones abusivas de fraude y estamos todos los días conociendo noticias a este respecto ahí están los datos

gobierno vasco datos oficiales están ahí y desde luego lo que yo no entiendo es que el partido que apoya al gobierno y este gobierno

ciudadanía vasca y sobre todo de cara a mejorar el sistema que como se ha visto es manifiestamente mejorable besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

hartzen ari da eta lehen esan dudan bezala desde el primer día que llegó al gobierno este el gobierno vasco está trabajando para revertir la situación del empleo para la empleabilidad a la que hacía referencia la señora garrido

tenemos un sistema de protección social importante que claro que es mejorable todo es mejorable y ahí tenemos ese acuerdo de marzo que fue aprobado también por este grupo y que como les he adelantado hay un borrados existente dando cumplimiento a ese mandato en el cual

porque eudel entendía que habiendo las elecciones era mejor esperar a que estuvieran constituidos los nuevos ayuntamientos

no entramos en ninguna complacencia señor maneiro el gobierno vasco lo que hace es actuar trabajar y dar los pasos dentro de las medidas porque como usted también

limitados pero está dando esos pequeños pasos que van

meses siempre hablábamos que aquí no se conseguía generar empleo y que el desempleo seguía creciendo bueno pues vayamos reconociendo también aunque sean pequeños y aunque todavía muchísimas personas en desempleo y todavía existen los datos también de pobreza de pobreza en general energética

de juventud de infancia etcétera pero se están dando pasos y vamos por el buen camino e instamos al gobierno a que continúe por dicha senda y respecto al partido popular señora garrido

las necesita las necesita tenemos una ley que es clara y que ustedes en el dos mil once cambiaron y que establece unos requisitos y unos tiempos

a solicitar estas prestaciones cuando no las necesita que hay caraduras en los sistemas pero en la sociedad no en este sistema de protección social en general pues puede ser y para eso se está trabajando y por eso hay unos controles y por eso lanbide está mejorando día a día también su funcionamiento

nos parece que usted sí que está haciendo flaco favor mezclando una vez más fraude con ayudas sociales

valer para poder tener para comer que tiene que acudir a los servicios sociales no creo que con esa estigmatización porque al final lo que están haciendo es estigmatizar y pretender hacer una comparación

cometen fraude sí al final es lo que queda es lo que queda señora garrido y ustedes

una y mil veces que no deben de hacerlo el sistema

bultzatzen badira jarrera xenofoboak en el punto anterior se han discutido medidas concretas a mí me gustaría en este ir más al fondo de la cuestión me gustaría hablar de principios de ideología a principios de este año

de residentes afroamericanos de vitoria que trabaja de forma reconocida por su integración en nuestra sociedad recibió amenazas por vía postal y también en forma de pintadas

se produjeron en un contexto determinado que no podemos obviar y ese contexto fue el que relacionaba determinados fraudes no con personas determinadas

de esas personas no era la primera ocasión que en euskadi y en otros lugares de españa un representante público relacionaba a los inmigrantes con el fraude y la delincuencia

así como al respeto de cualquier colectivo en particular es la difusión de estereotipos y de imágenes simplificadas sobre estos y esto es algo por desgracia ocurre con mucha frecuencia

de hecho este parlamento y también en ese contexto que señalo los socialistas propusimos una resolución en el pleno monográfico de noviembre sobre paro y pobreza

el parlamento rechaza cualquier intento de instrumentalización partidaria a partir de generalizaciones estigmatizaciones de colectivos o cualquier otro elemento que enfrente a la ciudadanía que pasa necesidades que solo pretenda debilitar y recortar el sistema de protección social y romper los equilibrios de la sociedad tolerante

está claro que ese pronunciamiento institucional no fue suficiente

la identificación del delito con el inmigrante está claro que se continúa alimentando la idea de que el que engaña es el diferente está claro que no se cortó con suficiencia el discurso que hace pensar a muchas personas que sus necesidades se deben a que otros vienen a llevarse lo que es de uno

y cuando eso no se corta con rotundidad se deja la puerta abierta

los responsables institucionales quienes ocupamos cualquier cargo público debemos zanjar cualquier duda incluso

debe ser inmediatamente corregido no puede pretenderse que se explique en un contexto sabemos mucho de esto en euskadi sabemos mucho de varias verdades y de muchas mentiras sabemos mucho de lo que es callar cuando se intenta excluir por razón ideológica

para que se elimine físicamente al despreciado políticamente no podemos permitir que se abra una nueva espita por la que circule el odio digamos las cosas claras digamos que este país euskadi se ha hecho grande gracias a las miles

de aquí y de fuera de nuestros territorios de otros lugares de españa

digamos que todos los que vinieron quisieron hacer una vida en un lugar donde veían oportunidades para hacerlo eso no quiere decir que no acudiera también quien quería aprovecharse del esfuerzo común

sino de su catadura moral como también hubo muchos autóctonos

de ese mismo esfuerzo digamos que vinieron más cuando más oportunidades hubo y que empezaron a volverse a sus lugares de origen cuando las oportunidades escasearon para todos

tienen iguales derechos iguales obligaciones que quienes nacimos aquí en vitoria en amoroto en castrojeriz o en cádiz iguales derechos iguales obligaciones las dos cosas y que quien incumple sus obligaciones afectando a los derechos de otro merece igual reproche y sanción haya nacido donde haya nacido

ciudadanos de un país todo lo demás son excusas temerarias para la convivencia no es cuestión de buenismo es cuestión de justicia nadie está protegido por su origen

del lugar de su nacimiento el delito no tiene nacionalidad

se han dado demasiadas circunstancias en que una raza nacionalidad o pueblo

casi siempre adversas de los autóctonos y sin ninguna excepción siempre se han cebado con los sectores más vulnerables de la sociedad

se utiliza a los que lo pasan mal contra otros que lo están pasando igual o peor solo se admite como beneficiarios del sistema

y a quienes asumen sus asimilación socio cultural este tipo de populismo tiene la habilidad

penurias que se soportan y condenar por ellas a los más débiles conocemos bien a quienes han venido a mejorar euskadi

cubrían los empleos no deseados por quienes aspiraban a vivir en la burbuja permanente y cuando la burbuja pinchó

y los nacidos fuera de aquí pinchó todo aquel que tenía un trabajo y lo dejó de tener pinchó el que ganaba un salario digno y lo dejó de tener pinchó quien cubría sus necesidades básicas y dejó de hacerlo y en euskadi resistimos mejor porque tenemos el colchón donde cae quien pincha en la vida

primeros paganos de este estallido lo vimos cuando se excluyó a los inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria primaria el anterior gobierno de euskadi el de patxi lópez puso pie en pared elevó la defensa

se nos dio la razón y quien promovió esa exclusión tres años después ha tenido que rectificar

cada recorte del sistema de protección al conjunto de la población que afectaba a los más débiles fue acompañado de una mirada específica

era la mejor forma de distraer las penurias de tantas familias culpar al de fuera en vez de culpar al gobierno ha sido una estrategia que ha tenido réditos en otros lugares de europa

xenófobos se han hecho un peligroso hueco político para poder manipular las emociones colectivas solo son necesarias coyunturas determinadas como la que en estos momentos se viven

en la actual situación de crisis económica generalizada de dudas sobre la capacidad de las instituciones y partidos para resolver los problemas sociales buscar el culpable de la situación en el otro en euskadi y en españa afortunadamente no han surgido partidos de ámbito general éxito electoral que hagan estrategia política con esos mimbres pero sí se han instalado esos discursos intolerantes y discriminatorios

es con respuestas institucionales rotundas no obstante a pesar de que como digo no se generalice ese rechazo

y estos apuntan a que en españa con la crisis han aumentado las personas que son reacias a la inmigración hasta un treinta y siete por ciento y hay un cuarenta y dos por ciento

son demasiado tolerantes también se destaca a ciertos colectivos como magrebíes o rumanos como los menos aceptados un informe

resalta que estos han crecido entre dos mil trece y dos mil catorce un diez por ciento y de ellos cuatrocientos veinticinco relacionados con el racismo en euskadi en dos mil catorce se han producido ciento cuarenta y uno denuncias por motivos delitos de odio el once por ciento del total de españa y de esas ciento cuarenta y uno ciento dos fueron de carácter racista teniendo en cuenta que este tipo de delitos por razones obvias no suelen ser denunciados deberíamos tomar seriamente en consideración estos datos

sienten su miedo quienes tenemos una responsabilidad pública tenemos que hacerles saber que no vamos a aceptar esa agresión y esa amenaza porque son agresiones y amenazas a todos a esta sociedad y a los valores en los que se asienta por ello nos parece importante el amplio acuerdo que hemos llegado

porque nos parece imprescindible que como decía antes la respuesta institucional debe ser rotunda

que este parlamento reprueba todas las expresiones acciones intimidatorias y ataques de carácter xenófobo y racista que este parlamento solidariza con la población inmigrante que ha sido objeto de este tipo de ataques que este parlamento

adquirimos un compromiso en la defensa y respeto a los derechos humanos que apostamos por una sociedad

y la cohesión social y que este parlamento vuelve a llamar a todos los representantes políticos para que destierren del debate discursos y afirmaciones xenófobas y racistas que atentan contra la convivencia e interculturalidad de muestra sociedad eskerrik asko

sí gracias presidenta llevamos años denunciando determinadas declaraciones y actitudes

inaceptables que se han dado en euskadi nosotros hace casi un año registramos una iniciativa que tiene bastante que ver con lo que hoy se debate nosotros en aquella iniciativa llamábamos la atención sobre determinadas declaraciones realizadas por el alcalde de sestao

además de asegurar en aquellas declaraciones que incumple la ley todos los días el regidor municipal añadió que la mierda ya no viene aquí

ya me encargo yo de que se vayan a base de ostias claro

el alcalde se convirtió en portavoz de todos los vecinos de sestao están hasta los cojones dijo de los rumanos y de los moros además amenazó con que desde el ayuntamiento se puede hacer mucho daño y señaló que no voy a prohibir que venga gente extranjera porque es imposible

que no venga a sestao gitanos buenos hay muy pocos estas barbaridades se dijeron en euskadi

del año pasado y este parlamento no dijo nada sobre la cuestión declaraciones absolutamente inaceptables que no pueden ser consentidas en una sociedad democrática estas declaraciones

y a pesar de que el alcalde pidió perdón y el partido nacionalista vasco rechazó por inadecuadas semejantes declaraciones el partido del que forma parte no lo expulsó de su organización cosa que en nuestra opinión es lo que tendría que haber hecho en aquella iniciativa que nosotros registramos en julio del año pasado

las declaraciones realizadas por el señor maroto alcalde de vitoria y decíamos que la pasada semana entonces el señor maroto declaró en una entrevista radiofónica que argelinos y marroquíes vienen a la ciudad para vivir de las ayudas

es escandaloso el alcalde y parlamentario vasco señaló que dos colectivos como los marroquíes y los argelinos utilizan las ayudas sociales para vivir sin tener que trabajar declaraciones todas ellas que recibieron el rechazo de todos los partidos políticos vascos menos el suyo que estos partidos políticos las palabras del regidor municipal como absolutamente inaceptables su formación política el partido popular sin embargo apoyó a su alcalde y evito exigirle ninguna rectificación y mucho menos censurar sus declaraciones es más desde entonces mantuvo su campaña durante meses

el partido popular lo pone como ejemplo de buen quehacer político estas declaraciones decíamos en aquella justificación son extraordinariamente graves

no podemos permitir que haya representantes políticos que traten de vendernos la idea de que es la inmigración la causante de la situación de crisis económica o desempleo que padecemos

obtener réditos electorales a través de discursos racistas y xenófobos estos discursos por tanto son inaceptables y deben ser censurados por cierto independientemente de los votos que arrastren son inaceptables en cualquier caso

en el resto de españa y en cualquier país europeo independientemente de los votos que arrastren estos discursos estas afirmaciones estas frases son absolutamente inaceptables y a partir de ahí presentábamos una proposición no de ley que finalmente no se ha llegado a debatir pero que viene al caso y que además algunos de sus puntos han sido recogidos en esa enmienda de transacción que ustedes han firmado y que nosotros evidentemente vamos a

hoy el grupo socialista nos trae nuevamente el debate consecuencia del ataque sufrido en una sede de una asociación de apoyo a inmigrantes

escritos amenazantes y humillantes recibidos en dicha sede compartimos el discurso realizado por el representante socialista compartimos lo que se dice en la justificación y compartimos también lo que se proponía en esa iniciativa más allá de que nosotros hayamos presentado

el texto original en todo caso ya digo que vamos a votar a favor de la transaccional por cierto espero que todos los grupos sin excepción apoyen ese texto transaccional

que tiene que ser así no tiene que haber ningún tipo de duda en relación a esto

sin embargo las declaraciones del señor bergara del señor maroto las únicas que nos han indignado durante los últimos tiempos el nacionalismo ha enarbolado también históricamente un discurso que pretendió dividir a la sociedad en dos los nacionalistas y los no nacionalistas los vascos de verdad

o los antivascos los de aquí y los de allá o los de fuera los representantes de los vascos los auténticos representantes de los vascos enviados desde españa a defender las ideas españolas estas cosas también se han dicho en este parlamento y fuera de este parlamento y durante los últimos tiempos por parte de ciertos sectores del nacionalismo vasco ciertos sectores se han pronunciado de esa forma o de forma semejante todo este rancio discurso presente en otros países europeos

no digamos ya en fin los ataques físicos a políticos no nacionalistas la persecución de los que no somos nacionalistas el discurso de la intolerancia la división o el odio en fin llegando incluso al asesinato de inocentes por parte de la banda terrorista eta

distinguiendo evidentemente los grados y las responsabilidades reivindicamos lo que vamos a reivindicar todos espero el respeto

la igualdad los derechos de ciudadanía el respeto al diferente la diversidad la integración o la cohesión social y se aprueba finalmente una transaccional

ese tipo de discursos absolutamente rancios e inaceptables

democrática insisto independientemente de los votos que arrastren en otros países europeos también determinados discursos discursos semejantes en algún caso discursos peores

nunca merecerá la pena un solo voto si viene precedido de un discurso semejante

votaremos a favor de la transaccional porque como digo todos somos seres humanos

todos somos iguales en dignidad todos somos de aquí independientemente del lugar donde nos encontremos todos somos de aquí y

afroamerikanoen elkartean jaso ziren no falta trabajo sobran inmigrantes

ayudas sociales para los nacionales esbastikarekin batera ikusten den bezala enpleguarekin langabeziarekin

eta hau onartezina da kezkagarria da gainera oso kezkagarria y es el medio de esta campaña interesada sobre la concesión de ayudas sociales a inmigrantes donde aparecen pegatinas con las cruz esvástica nazi en la citada asociación de residentes

de estos inmigrantes y favorecer su integración asociación que lleva nada menos que veintiuno años trabajando en gasteiz pero además durante estos meses se ha puesto a unas personas en contra de otras por razón de su origen algunos inmigrantes señalan que notan las miradas recelosas de algunas personas incluso se ha puesto a unos inmigrantes en contra de otros

y estos que son otros cualquiera da igual pero siempre unos en contra de otros en estos tiempos en los que hay muchas personas y familias

en paro y cuando los niveles de pobreza han aumentado considerablemente es fácil poner a unos

sobre todo en contra de los inmigrantes fomentando el racismo y la xenofobia pero es una gran irresponsabilidad imperdonable políticos inciten a ello por sus manifestaciones y actos no es nuevo antes también se ha mencionado estamos viendo lo que viene sucediendo

nazi antes se ha dicho también que este país nuestro país

entre todos y todas y por eso es necesario que desde las instituciones desde este parlamento desde el ámbito político denunciemos estas actitudes que fomentan el enfrentamiento y la xenofobia y trabajemos a favor de una sociedad donde la pluralidad y la diversidad sean valoradas de manera positiva

baitira la aparición de las pegatinas y el envío de escritos amenazantes en todo caso nos parecen reflejo de un comportamiento denunciable que en nada ayudan a la convivencia e interculturalidad de nuestra sociedad

para siempre además en el caso concreto que nos ocupa hoy los ataques a la asociación afroamericana atentan contra el colectivo de inmigrantes uno de los eslabones más débiles de la sociedad no compartimos los estereotipos que se han venido utilizando para marginar en general

son personas que habiendo decidido abandonar sus países de origen seguramente porque la situación era insostenible en los mismos optaron por venir a vivir a euskadi para desarrollar aquí su proyecto de vida creemos

hemos de desterrar del debate político discursos y afirmaciones xenófobas y racistas insistimos en nada benefician a la convivencia de nuestra sociedad máxime cuando la sociedad vasca siempre se ha caracterizado por ser solidaria por ayudar a aquellos que peor lo están pasando por ser hospitalaria con todas las personas

abandonar sus países de origen han venido a vivir a euskadi creemos que estas señas de identidad de nuestra sociedad

y para ello nos parece imprescindible que los y las políticas seamos exquisitos con el lenguaje que no dejemos ningún resquicio que pueda generar dudas respecto a nuestra posición totalmente contraria

y solo quería hacerle una referencia al señor maneiro después de haberle escuchado su primera intervención porque creo que discursos como el suyo tampoco ayudan mucho a la convivencia

pero se acaba de marchar pero de todas formar se lo voy a decir para que lo pueda leer en el acta

de solucionar los problemas que tiene en su propio partido que además son

hablaba del respeto a la igualdad del respeto a la dignidad de que todas las personas somos iguales en dignidad por lo tanto lo que no entiendo es porque usted no ha firmado

eskubidearen bermea dela como decía la salvaguarda de los derechos fundamentales es uno de los principios inherentes y básicos de la unión europea

los convenios internacionales el convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales la carta de los derechos fundamentales de la unión europea funde en un mismo documento los derechos fundamentales reconocidos por los tratados comunitarios los principios constitucionales comunes de los estados miembros el convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y las cartas sociales de la unión europea y del consejo de europa

de los derechos fundamentales se reúnen en un mismo texto todos los derechos de las personas se reconocen derechos entorno a una serie de principios básicos que impregnan todo el funcionamiento de la unión europea y de las diferentes

democráticas la dignidad humana las libertades fundamentales la igualdad la solidaridad la ciudadanía y la justicia con la adopción del tratado de lisboa

jurídicamente vinculante y se dispone que la unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana libertad democracia

estos son señorías valores comunes a los estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo la no discriminación la tolerancia la justicia

y mujeres por lo tanto la unión reconoce los derechos libertades y principios enunciados

esta carta de los derechos fundamentales de la unión afirma que sitúa a la persona y a la dignidad humana en el centro de su actuación europar batasunaren

el tratado de funcionamiento de la unión europea en su artículo décimo hace referencia a la lucha contra la discriminación el artículo dos de la declaración de los derechos humanos se señala que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política

económica el artículo uno de nuestra constitución en el título preliminar habla de que españa se constituye en un estado social y democrático de derecho

la justicia la igualdad y el pluralismo político en los artículos en los que se hace referencia en el apartado de los derechos y deberes fundamentales en el

se señala que la dignidad de la persona los derechos inviolables que le son inherentes el libre desarrollo de la personalidad en respeto a la ley a los derechos de los demás son fundamento del orden político

en el artículo catorce se señala que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimientos

o cualquier otra circunstancia o condición personal y social por lo tanto podemos concluir leída toda estos artículos y la referencias legales

en los principios que impregnan todo el funcionamiento de la unión europea y de las instituciones

religioso desde luego constituyen una clara violación de los derechos fundamentales y de las libertades de los derechos humanos y de las libertades fundamentales arrazakeriaz xenofobia

por lo tanto uno de los principios como decía que guía la actuación de nuestras instituciones democráticas es garantizar el respeto a la dignidad humana y en consecuencia a la lucha contra la discriminación

kontra jasotzen duen ekintzak gaitzestea en el partido popular creemos firmemente en todos estos valores y desde luego

nuestra actuación política la actuación de todos los representantes institucionales del partido popular el escrupuloso respeto a los derechos humanos

o los vulnere luchar contra la discriminación es un compromiso de todos así como evitar

estigmatizaciones de cualquier colectivo la construcción de una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y en la solidaridad

en esta tierra en la elección de sus opciones de vida y en su plena realización personal con plena igualdad de los derechos defendemos por lo tanto en el partido popular una convivencia pacífica que respete la pluralidad la diversidad y la cohesión social sabemos mucho en euskadi de lo que son los ataques a los más elementales derechos a la libertad a la vida sabemos lo que representa la amenaza de

vidas por delante por eso es una oportunidad para renovar el compromiso con los derechos humanos en mayúscula pero con todos los derechos humanos nosotros como no podía ser de otra forma vamos a apoyar la enmienda de transacción suscrita por todos los grupos con representación en esta cámara tengo que decir que inicialmente no presentamos enmienda a la iniciativa original porque estamos de acuerdo con ella porque precisamente creemos que son esos principios los que deben de guiar la actuación política y son los que debe

pero también nos hubiera gustado ir más allá y nos hubiera gustado que otros grupos con representación en esta cámara hubieran exigido

la valentía de condenar el totalitarismo la amenaza terrorista hubiéramos hecho una condena y una defensa de los derechos humanos en mayúscula porque efectivamente aquí se han hecho muchos discursos que han tratado de dividir a la sociedad y se han acometido muchas acciones desde luego que han tratado de eliminar a parte

un debate en toda su magnitud y haber hablado de los derechos humanos en mayúscula sí señor unzalu hablamos de principios

estar en contra del pronunciamiento hoy en esta cámara y por eso como le digo no presentamos una enmienda a su iniciativa original

quiero hacer una referencia a aquellos grupos que han intentado mezclar debates traer aquí declaraciones que no vienen a cuento sobre

causa abierta contra el señor maroto y han sido en cualquier caso las denuncias planteadas archivadas por lo tanto creo que la cuestión está

eskerrik asko me alegro sinceramente de que la enmienda transaccional a la que hemos llegado vaya a ser

por esta cámara creo que no debería de ser de otra manera

que he dicho en mi primera intervención porque cuando hablamos de que todos luchamos contra la discriminación o que estamos a favor de la convivencia política como en la última intervención ha dicho la señora garrido yo creo que hay que recordar y debemos recordarnos todos los días todos nosotros y a todos nuestros dirigentes que una de los mayores daños que se puede hacer a la convivencia

de determinados colectivos es la simplificación la estigmatización de ciertos colectivos

nosotros en la primera intervención lo que decía yo decía es que debemos tener todos los responsables públicos muchísimos cuidado con esta cuestión ni los magrebíes

quieren vivir de las ayudas ni los rumanos son delincuentes ni los gitanos son basura cuando décimos eso estamos

estamos metiendo a un colectivo y estamos haciendo repercutiendo eso a la sociedad

decir que son delincuentes o que hay un fraude de un colectivo el fraude no tiene nacionalidad el fraude lo cometen las personas y eso tampoco se puede hacer y se hace con demasiada frecuencia con demasiada frecuencia se incita a que un cierto colectivo es el que comete el fraude en las ayudas sociales a nadie se nos ha ocurrido decir que el fraude fiscal se

esa hipocresía es la que estamos trasladando muchas veces a la sociedad identificando con ciertas cuestiones identificando estigmatizando a ciertos colectivos

acusamos a un colectivo de que delinque estamos cometiendo el gravísimo error y estamos yendo en contra de esa convivencia

estamos haciendo un flaco favor a la lucha contra la discriminación

que creo que todos tendríamos que tener bien presente tendríamos que exigir exigirnos

y tendríamos que controlar dentro de los partidos y en la propia sociedad insisto me alegro

de que el acuerdo al que hemos llegado entre los grupos que firmamos la

pero creo que esto no nos debe olvidar y no nos debe dejar pasar el que esta es una labor que no se acaba hoy que no es una labor que se hace con una resolución parlamentaria sino que es un trabajo

una actitud que debemos mantener a lo largo de toda

que prendió la mecha del racismo ez ez irakurtzen ari naiz

tiene fecha de origen según las asociaciones de inmigrantes consultadas

gorka moreno director del observatorio vasco de inmigración ikuspegi

la cita electoral sin embargo son los políticos los que abren la espita para que ciertas personas

alas hay que tener mucho cuidado con esos espacios de impunidad porque agrietan la convivencia y los políticos son los únicos que pueden cerrar esos espacios

que desde la formación exigen un cambio de actitud a quienes como maroto están contribuyendo con su discurso a generar conflicto

que declaraciones y actuaciones irresponsables como las de maroto abonan el terreno a la comisión de este tipo de actos que tienen como objeto a la población inmigrante

partido popular todos tenemos muy claro cuáles son los principios que he enunciado que impregnan que guían la actuación de nuestras instituciones esos principios que son la base de la unión europea del funcionamiento de nuestra democracia como son el respeto a los derechos humanos

el pluralismo la no discriminación la cohesión social y la solidaridad por lo tanto como eso es así tenemos la firme convicción de eso ninguno podemos promover

y la estigmatización de ningún colectivo y mire señores de eh bildu desde luego de estigmatizaciones pueden hablar muchos colectivos por desgracia en la sociedad vasca podríamos hablarle

durante mucho tiempo en esta sociedad esas estigmatizaciones a las que ustedes toda esta bancada han mirado

para otro lado y les vuelvo a repetir ustedes hoy pierden una oportunidad una nueva oportunidad de hablar

a los derechos humanos en mayúsculas esa petición que siempre les está haciendo la sociedad vasca y a las que ustedes siguen haciendo oídos sordos por lo tanto legitimidad para hablar de algunas cuestiones poca cuando no pueden hablar de derechos humanos de la defensa de los derechos humanos

porque siguen sin condenar lo que ha sido la vulneración en esta tierra del derecho fundamental de muchas personas como es el derecho a la vida y a la integridad física

buenos días gracias señora presidenta lehendakari consejeros señoras y señores parlamentarios

oportuna procedente una iniciativa sobre venezuela sobre la situación

en un caos político institucional

económico social más lejos un caos en relación con lo qué es el respeto

lo qué es el respeto a los principios democráticos hemos alcanzado un acuerdo mayoritario sobre una serie de declaraciones muy sólidas en relación

los cuatro grupos firmantes de la enmienda de transacción

de dos mil catorce sobre la persecución a la oposición democrática en venezuela del parlamento europeo

de doce de marzo de dos mil quince o sea muy reciente sobre la situación de venezuela

también sobre la situación de venezuela es decir que las instituciones democráticas europeas están muy preocupadas en relación con ese

en venezuela lo cierto también es que mejores y más claros pronunciamientos los mejores que ha habido son en ese sentido los del parlamento europeo

los recientes pronunciamientos del secretario general de naciones unidas

sobre la preocupación por los incidentes violentos y la pérdida de vidas humanas en venezuela y la de ayer mismo de la oficina

por las condiciones de detección y deterioro de la salud de daniel ceballos

las más diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos tienen hechos públicos informes demoledores sobre la violencia sobre la impunidad

en venezuela nosotros mi grupo había presentado una proposición no de ley a ella se sumó una proposición no de ley que después presentó el grupo nacionalistas vascos en relación con las mismas cuestiones

y hemos profundizado y hemos hecho nuestros esos pronunciamientos parlamento europeo en concreto yo en mi iniciativa en veintisiete de febrero todavía no estaba el siguiente pronunciamiento en marcha aunque sí se perfilaba

de la oposición democrática en venezuela decía muchas cosas demoledoras pero entre otras decía que considerando que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son elementos fundamentales de la democracia y está reconocidos en la constitución venezolana que la igualdad y la justica para todos resultan

y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos que existen numerosos informes que confirman que los medios de comunicación sufren cada vez más intimidaciones y censura cada vez más estricta

esta organización declaró que venezuela está sometiendo a una gran presión a los medios independientes se insta

y se advertía en esa misma asamblea el deterioro progresivo

de las libertades democráticas también consideraba esa resolución

con falsas acusaciones de instigación a la violencia a la conspiración de incendio provocado de daño a la propiedad

sinfín de falsedades y desde su detención les constataba que ha padecido torturas físicas y psicológicas

también como a los alcaldes de la oposición daniel ceballos vicencio

han sido detenidos por no haber logrado poner fin a las protestas y la rebelión civil en sus ciudades condenados a varios años de prisión que los congresistas también como caldera garcía

es decir la persecución política pura y dura además se consideraba que dirigentes estudiantiles

centro de estudiantes de la escuela de trabajo social de la universidad central de venezuela

en dependencias de los servicios bolivarianos de inteligencia y se les han practicado torturas tratos degradantes en relación con las propuestas ocurridas en febrero y mayo de dos mil catorce siendo acusados de delitos de instigación a delinquir y uso

vamos más lejos el alcalde de caracas antonio ledezma ha sido

encarcelado y la violencia en la represión de las manifestaciones pacíficas ha tenido muchas víctimas mortales entre ellas hay que recordar la del joven de catorce de la kluivert roa berroa

en la cabeza por la policía bolivariana durante una propuesta en san cristóbal en la que el niño no participaba

de testimonios de realidades de dramáticas de realidades brutales en relación con dónde se mueve el régimen de venezuela del

las propias declaraciones del parlamento europeo hablaban presidente maduro

la última declaración de doce de marzo ha realizado asimismo rocambolescas denuncias de supuestas conspiraciones extranjeras

ocasiones de acusaciones sin fundamento implicación en supuestos planes para provocar inestabilidad

criminalizar a los líderes de la oposición política y debe garantizar precisamente lo contrario

brilla por su ausencia en este momento y desde hace tiempo en venezuela además

y en esos considerandos pues está el hecho de que venezuela es el país que cuenta con reservas energéticas más importantes de américa latina y que paradójicamente el pueblo venezolano

una gravísima escasez de artículos de primera necesidad que los precios de los alimentos se han duplicado que ha aumentado el racionamiento de los alimentos

el fracaso institucional el fracaso político el fracaso de defensa de los derechos humanos el fracaso social

están ahí en reiterar la profunda preocupación como haremos nosotros desde luego

pedir a las autoridades venezolanas que liberen inmediatamente a antonio ledezma a

y a tantos y tantos manifestantes pacíficos y líderes políticos estudiantes opositores detenidos arbitrariamente por ejercer

derechos fundamentales hay que pedir a las autoridades de venezuela que velen

su preocupación por el estado de salud de alguno de los detenidos arbitrariamente desde luego en esos pronunciamientos

del niño roa y de seis estudiantes más y desde luego transmitiendo el pesame a las familias y desde luego

venezolana y sus obligaciones internacionales y sobre todo en lo que respeta a la independencia judicial

y que están permanentemente vulnerados perfectamente masacrados en venezuela

el pronunciamiento que hacemos en el parlamento es claro

bien a todo a ello además a todos esos pronunciamientos del parlamento europeo secretario general de naciones unidas del alto comisionado de la onu para los derechos humanos pues bueno hay que sumar la declaración

exjefes de estado y de gobierno una declaración clara

constatar esa situación de deterioro

pues esa severa crisis democrática institucional económica

y pensar en el futuro de esa nación es decir esa declaración de panamá fue también suscrita el nueve de abril de dos mil quince así que todas las declaraciones a las que nos estamos refiriendo

desde el parlamento europeo a las organizaciones de defensa de los derechos humanos pasando por la

de relevancia política son recientes es decir

que las organizaciones que agrupan a los estados americanos bien este parlamento además

solidario con el pueblo de venezuela y yo creo que trasladando este tipo de planteamientos en relación con la denuncia de la falta de democracia y de respeto a los derechos humanos lo que hacemos es solidarizarnos con el estado de venezuela como también lo hacen las declaraciones del parlamento

y este parlamento siempre ha sido solidario con el pueblo de venezuela y tengo que recordar ya en mil novecientos noventa y nueve esta cámara aprobó una declaración institucional con motivo de las inundaciones y aquellas lluvias torrenciales en la catástrofe ocurrida y se solidarizaba ahora nos seguimos

con un pueblo devastado desabastecido un pueblo que en este momento no tiene futuro el gobierno de maduro no ha transmitido un mensaje de condena de la violencia y esos mismos observadores internacionales que hablan de esta cuestión dicen que no se investiga

resarce a las víctimas no hay independencia del sistema judicial son cuestiones que

no nos las inventamos nosotros lo dicen todo tipo de organizaciones de defensa de los derechos humanos

internacionales y en ese sentido lo décimos también desde el parlamento vasco muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

la república bolivariana de venezuela vive tiempos muy complicados una situación económica crítica que termina además

el aumento de la pobreza y una carencia de productos sanitarios y alimentarios de primera necesidad para su ciudadanía

comente algunos datos sobre venezuela el fondo monetario internacional

económica de toda latinoamérica y que en el dos mil quince

va a registrar una caída potencial del siete por ciento y que además la inflación se va a disparar hasta el noventa y seis coma ocho por ciento a finales de este año no hay productos de higiene personal no hay aceite no hay leche no hay huevos

y en venezuela falta de todo pero sobra violencia por todos los costados si miramos el informe de diciembre de dos mil catorce del observatorio venezolano de violencia venezuela termina el año dos mil catorce siendo el segundo país del mundo con más homicidios

y hasta la llegada de hugo chávez al poder en mil novecientos noventa y nueve cierto que venezuela tenía una situación de delincuencia común y de violencia bastante alta y mucho más alta

pero por lo menos tenía una situación estabilizada y por debajo de la violencia de colombia de brasil de el salvador o del mismo méxico y sin embargo en caracas

realizada por el propio gobierno se tuvo una tasa de homicidios de doscientos treinta y dos personas muertas asesinadas por cada cien mil habitantes creo recordar que en euskadi estamos en el cero coma cuarenta y cinco

después del año dos mil diez no se publicaron más datos venezuela ha obtenido diecinueve puntos en el índice de percepción de la corrupción

que se han analizado y con esta puntuación venezuela se sitúa entre los países que mayor corrupción pública tiene

y por ejemplo en el año dos mil cinco venezuela se declaró de analfabetismo lo cual según la unesco quiere decir que menos del cuatro por ciento

significativo para una sociedad y también es cierto que durante los primeros años del gobierno del presidente hugo chávez los programas sociales de vivienda y de alimentación permitieron entre otras cosas que se redujera la pobreza de treinta coma cinco por ciento de la población en dos mil tres a veintitrés coma cuatro por ciento en el año dos mil seis y cuando hablamos de pobreza en venezuela estamos hablando de gente que vive con menos de un dólar al día

panorama social de américa latina dos mil catorce que

establece que entre dos mil doce y dos mil trece la tasa de pobreza en venezuela

al treinta y dos coma uno y esto otra vez es una marcha atrás y es situarse otra vez a números del año dos mil uno y dos mil dos

ha variado enormemente a lo largo de estos últimos quince años pero yo recuerdo perfectamente cuando llegó

la media de estos últimos quince años ha sido un barril de petróleo a sesenta y cuatro coma veintisiete dólares en la referencia que utilizan los venezolanos que es el barril tejano con puntas de ciento cuarenta y seis coma nueve dólares venezuela es un productor y exportador de petróleo y el noventa por ciento de las divisas vienen de su petróleo por lo tanto

han tenido más que dinero suficiente para cometer todas las reformas sociales que necesitaba el país porque sí las necesitaba desde hace mucho tiempo y que sin embargo no ha logrado

y acometer los cambios que necesitaba y además de esta situación hay una enorme crisis política que se manifiesta en la conculcación de los derechos humanos

persecución y hostigamiento político de la oposición y

una situación crítica a nivel de economía de seguridad y socialmente profundamente

la comunidad internacional en general pero especialmente la comisión de derechos humanos

de la onu así como la oea la organización de estados americanos pero también

el señor carmelo barrio han realizado numerosos llamamientos al diálogo al respeto de los principios democráticos y de los compromisos internacionales de venezuela en materia de derechos humanos han denunciado ya se ha dicho la dependencia gubernamental del poder judicial y también las detecciones arbitrarias de leopoldo lópez antonio ledezma

numerosos opositores así como también ataques a la libertad de expresión libertad de prensa represión desproporcionada de manifestaciones pacíficas

se autoriza y se justifica la disolución de manifestaciones con armas

otros informes recientes sobre la situación de los derechos humanos

también denuncian las graves vulneraciones de los derechos humanos en venezuela

fue un año de movilizaciones se iniciaron en febrero con una ola de protestas conocidas como la salía promovidas por la mesa de unidad democrática liderara por leopoldo lópez maría colina machado y antonio ledezma la tensión generada fue muy fuerte como consecuencia de aquellas movilizaciones y sin consiguiente represión

se produjo la irreparable pérdida de vidas humanas el más escandaloso el caso del adolescente de catorce años kluiverth roa asesinado por un policía otras cuarenta personas

sienten que no se ha hecho justicia las denuncias sobre el control que el gobierno ejerce sobre la justicia son constantes la represión

se cebó con los líderes de la oposición y muchos participantes en aquellas manifestaciones fueron detenidos y aún hoy siguen encarcelados

en espera de juicio y sesenta y nueve de ellos en la cárcel tanto desde organismos internacionales como

o el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos o la comisión interamericana de derechos humanos como desde organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como

el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y de miembros de la guardia nacional así como la participación en los sucesos de grupos armados paragubernamentales la denuncia se amplía el hecho de que no se haya investigado y exigido responsabilidades por tan graves acontecimientos en vez de abrirse al diálogo

ha adoptado medidas restrictivas y de limitación de las libertades básicas

que permite al ejército el uso de armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas que va en contra de la propia constitución

el control de las diferentes instituciones del estado de derecho es otra de las obsesiones del gobierno de nicolás maduro el legislativo el ejército y el poder judicial están manipulados y subyugados al ejecutivo otra cruzada se a abierto por el control de los medios de comunicación los medios públicos son voceros sin más

por otra parte el gobierno ha tratado mediante operaciones de compraventa controlar medios privados como globovisión y por último

se enfrentan a la ley resorte de responsabilidad social de los medios de comunicación que establece cómo a de ser la comunicación en los diferentes medios

si no quieren arriesgarse a una multa como decía

la brecha se ha abierto aún más cada día que pasa el aislamiento internacional del gobierno de maduro es mayor y los descontentos en venezuela más numerosos

con un sesenta y ocho por ciento de encuestados que valoran negativamente la acción del gobierno

precisamente más del cincuenta por ciento de los venezolanos espera que se moderen las posiciones del gobierno y oposición para lograr un diálogo

a finales de este año se celebrarán elecciones legislativas en venezuela y creemos que en ellas debe garantizarse la participación de todos los actores democráticos a los que pedimos

del ordenamiento constitucional y agrave la situación de desencuentro

que esas elecciones fueran el inicio de un nuevo proceso político integrador basado en el consenso un nuevo período en el que todas las fuerzas democráticas asuman la responsabilidad de afrontar el futuro la polarización política el enfrentamiento y la inseguridad son problemas evidentes en venezuela

se está convirtiendo posiblemente en el problema fundamental del país un país con unos recursos naturales inmensos que debiera ser uno de los motores de desarrollo de la zona está hoy agobiado por una que según algunos informes se espera que en dos mil quince supere incluso el ciento treinta por ciento la debilidad de su moneda el bolívar

que están haciendo cotidianas las colas ante supermercados y centros de abastecimiento todo ello provocado por la bajada de los precios del petróleo

con el que habían dirigido la economía los gobiernos de chávez y maduro un problema

desde el propio chavismo han aflorado síntomas de profundas divisiones poco conocidas hasta entonces la carta

que criticó la realidad económica y las luchas de poder en el gobierno de nicolás maduro

y la salida de héctor navarro de la dirección del partido socialista unificado de venezuela

o las cada vez más duras declaraciones de los portavoces de marea socialista

todavía dentro de las filas chavistas son ejemplos de esta división

ante una situación tan delicada el parlamento europeo aprobó una resolución por amplia mayoría el pasado doce de marzo en la que están incluidos los puntos de la enmienda transaccional firmada por los grupos de esta cámara por eso nuestra enmienda

en todos sus términos a aquella declaración se ha incluido también la declaración de diciembre y en este sentido tengo que agradecer

que hayan accedido a hacer esta declaración genérica sobre algo

los grupos mayoritarios en el parlamento europeo del que formamos parte también los grupos que hemos firmado

esta enmienda transaccional en aquellas resoluciones del parlamento europeo

se solicita la liberación de los opositores se condena la detención arbitraria del alcalde de caracas antonio ledezma y se hacen votos para que en el futuro en vez del enfrentamiento impere el diálogo

sobre la situación en venezuela queremos hacer un llamamiento a la cordura al diálogo desde el respeto a todas las ideologías y posicionamientos políticos tanto a los que mantiene la oposición democrática como a los que mantiene el gobierno legítimo

que no reconocen al contrario nosotros apostamos por la recuperación de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición que desgraciadamente se cerró sin alcanzar logro alguno consideramos fundamental para resolver esta situación fomentar el diálogo fortalecer las instituciones del país

sí gracias presidenta venezuela es a día de hoy una dictadura donde se violan a diarios los derechos humanos se persigue y se encarcela

a la prensa siendo esto así es evidente que votaremos a favor de la transaccional que se ha firmado y quienes no voten a favor de esa transaccional que hemos firmado una mayoría de grupos estarán diciendo con su voto que están a favor de que en venezuela

ya en diciembre de dos mil catorce el parlamento europeo aprobó una resolución para condenar la persecución de la oposición en venezuela y los constantes ataques a su democracia que poco o nada dista de la resolución aprobada después

de dos mil quince estamos hablando de vulneraciones de derechos humanos estamos hablando de

de fuga de inversiones de desabastecimiento de productos básicos de inseguridad ciudadana venezuela es el segundo país con más homicidios del mundo

estamos hablando de persecución de los opositores políticos democráticos

y de brutal represión ejercida contra la población por parte del gobierno de esta dictadura estamos hablando de detección arbitraria de oponentes y opositores políticos

de torturas físicas y psicológicas estamos hablando de tratos degradantes que sufren miles de ciudadanos estamos hablando de existencia de

de la brutal violencia represiva contra los manifestantes estamos hablando de falta de independencia judicial de corrupción absolutamente impune

lo confesó en un programa de televisión se han producido ciento cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho asesinatos desde mil novecientos noventa y nueve

en mayo en distrito capital la cifra además representa un incremento del once por ciento con respecto al total de muertes violentas de mayo en dos mil catorce en promedio fueron llevados a la morgue quince cadáveres todos los días del mes la mayoría fueron casos de homicidio aunque también hubo algunas por accidentes suicidios y causas por determinar estamos hablando de una situación de pobreza que hace la vida imposible a miles de venezolanos en las últimas cifras oficiales difundidas

la pobreza se había incrementado en un seis coma siete por ciento lo que significó que un total de cuatrocientos dieciséis mil trescientos veintiséis hogares

que padecen a diario la exclusión social en dos mil catorce la tasa de inflación general fue del sesenta y ocho por ciento y en el sector de los alimentos

las proyecciones económicas para dos mil quince sostienen que la inflación general superará el cien por ciento hablamos de una severa disminución de ingresos públicos de dependencia de importaciones para cubrir necesidades básicas creciente devaluación de la moneda que genera elevados índices de inflación

más que tendencias antidemocráticas y autoritarias expresadas en la negativa del estado a un diálogo plural y democrático con todos los sectores de la sociedad

estamos hablando del país con mayor inflación del mundo que sufre una dramática situación de sus finanzas

adquisitivo hablamos de inflación desbocada de escasez y de desabastecimiento de toda clase de bienes hablamos de escasez de alimentos básicos y de dependencia alimentaria de racionamiento de alimentos y de falta de medicinas y todo ello a pesar de ser

de petróleo tendría dinero más que suficiente para garantizar el bienestar al conjunto de la sociedad pero ese dinero se lo ha llevado un gobierno dictatorial y corrupto esto escribió mi amiga venezolana yedzenia en su blog

seis de febrero de dos mil quince dicen que ojos que no ven corazón que no siente y probablemente eso es lo que pasa en el mundo cuando los venezolanos contamos lo que padecemos cuando décimos lo que ocurre en el país parece que contáramos una historia de terror o de ciencia ficción nos miran raro a veces hasta con incredulidad piensan que somos presa de los sentimientos y por eso exageramos

cada vez es más difícil explicar como un país tan rico está hundido en la más profunda de las desgracias conseguir que nos crean que un kilo de pollo cuesta al cambio unos sesenta euros y sobre todo hacer entender el sistema cambiario venezolano es más complicado que resolver problemas de trigonometría

el cerebro y si a eso le sumamos el alto nivel de represión a los medios de comunicación que aún

donde cualquier ciudadano puede ser encarcelado por el simple hecho de fotografiar una de las humillantes colas para comprar comida mientras que los efectos al régimen se autocensuran mostrando un mundo bonito y multicolor como si venezuela fuera el escenario de un cuento de hadas la cuestión se convierte en misión

las fotos que circulan por la red requieren ser revisadas una y otra vez para poder asegurarnos de su autenticidad y si no hay forma de comprobarlas o no vienen de una fuente de confianza es mejor no difundirlas este miércoles aprovechando la ausencia de sus hijos y en compañía de una amiga

intentamos evitarle a toda costa hacer una cola de muchas horas para comprar comida

el habernos cuidado hasta convertirnos en personas de bien es ahorrarles cualquier tipo de penurias sin embargo

y mucho menos a obedecer a sus hijos bueno

lo hace quién puede decirle a una sexagenaria que no haga cola para ver si encuentra

con el número trescientos cincuenta y dos en el brazo como si se tratara de ganado en venta o de una esclava del siglo dieciocho mi madre pudo al supermercado consiguió hacer varias fotos de la cola y de la abominable marca de tinta que recuerda tragedias antes ajenas a nuestra tierra el local daba vergüenza distaba mucho de esos en los que ella tantas veces hizo la compra para nosotros y donde los anaqueles repletos de productos de diferentes marcas

distaba mucho de esos que le hacen saltar las lágrimas cuando está fuera del país

esos tres números mi mamá no se merece esto ningún ser humano se lo merece es lamentable

no ser aplastado en una avalancha de gente desesperada por pollo

de modo que cuando por fin llegó a casa sintiéndose indignada por padecer el resultado

y al mismo tiempo afortunada porque tuvo la suerte de volver sana salva y con artículos que en plena escasez se hallan cada vez con más dificultad publiqué la nota

que han arruinado este país trescientos cincuenta y dos son dos números más que el artículo de la constitución que desde hace mucho tiempo todos los venezolanos deberíamos aplicar

que se han permitido el uso de autorizar el uso de armas de fuego contra quienes protestamos

a aplaudir como focas trescientos cincuenta y dos son los días que hasta ayer cinco de febrero

llevaba preso leopoldo lópez trescientos cincuenta y dos son los millónes de maldiciones que han caído sobre el régimen que espera resolver la escasez con el maná que según ellos dios proveerá

a la limosna internacional porque las ganancias de quince años de la mayor renta petrolera de nuestra historia no han sido suficiente para cubrir tanta codicia despilfarro y corrupción trescientos cincuenta y dos son los años de cárcel que espero le caigan a todos los responsables del régimen que ha inundado de miseria nuestras calles trescientos cincuenta y dos son menos de la mitad de los contenedores de alimentos podridos que se encontraron solo en los almacenes de la productora y distribuidora venezolana de alimentos

de dos mil diez trescientos cincuenta y dos es el número que no representa ni la milésima parte de las toneladas de comida que se han perdido ni de los millardos de dólares que se han regalado trescientos cincuenta y dos son los cadáveres que superan las tres cuartas partes de los ingresados este enero

monte en fin trescientos cincuenta y dos para estos mezquinos

en una ciudad más de este gran país destrozado que no les importa para otra cosa que seguir el poco jugo que le queda un número que refleja la realidad que por más cadenas por más represión por más amenazas que nos hagan no pueden ocultar porque el sol no se puede tapar con un dedo y aunque venezuela está viviendo sus horas más oscuras

está por llegar una vez más gracias mama efectivamente esperamos que se cumpla la constitución de venezuela y en concreto su precioso artículo trescientos cincuenta que dice lo siguiente el pueblo de venezuela fiel a su tradición republicana a su lucha por la independencia

desconocerá cualquier régimen legislación o autoridad que contraríe los valores principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos

artículo pueda cumplirse cuanto antes y el pueblo venezolano
se libere de esta cruel represión gracias eskerrik asko maneiro jauna

aquí representada y como colaboradores de la campaña de desprestigio y manipulación que existe contra el gobierno legítimo de venezuela suman sus fuerzas al ideario golpista

ez zaizue ardura hoy asistimos en esta cámara a un ejercicio de intrusismo político en defensa de la derecha golpista venezolana cuántas iniciativas han cursado ustedes señores del pp y pnv en relación a otros países del mundo ustedes del pnv solo han cursado dos iniciativas en relación a política internacional para pleno y son ucrania y venezuela

se alinean con dos golpes de estado y con aquellos que defienden los golpes de estado esa es la estrategia del gobierno vasco en relación a la política internacional apoyar golpes de estado y a los golpistas dígame las razones por las que no hablan ustedes ni de méxico ni de colombia con opositores asesinados todos los días ayer mismo asesinaron a un candidato en méxico del prd y van nueve

asesinados dígame las razones a ver si las entiendo porque las que a mí se me ocurren pasan porque ustedes están alineados con quienes permiten esas actuaciones se identifican con el poderoso y no con el débil con el neocolonialismo y no con la justicia de los pueblos ustedes buscaban que fuesemos nosotros

ustedes los defensores de la derecha golpista los firmantes de la transacción venezuelak beste herrialde askotan gertatzen

con el desabastecimiento incluso con la corrupción política y yo no los voy a negar sin embargo no es menos cierto que por lo menos cierta información se puede rebatir fácilmente así y leo datos de este mismo mayo en los últimos siete meses solamente en la frontera con colombia se han incautado por tráfico ilegal de contrabando cuatro mil ochocientos treinta y siete toneladas de productos alimentarios

etcétera quiénes están provocando estos desabastecimientos creo que ustedes lo saben y lo saben muy bien son aquellos a quienes defienden hoy aquí

y leo textualmente lo reitero una vez más mientras se siga atacando a la empresa privada no habrá producción y como consecuencia

la derecha golpista venezolana es responsable del desabastecimiento que vive la población civil y provoca que miles de personas no tengan recursos básicos por cierto que nadie se olvide que antes de los gobiernos de chávez

a manifestarse en las calles y a saquear comercios para poder subsistir

y es que la gran deuda externa contraída por el país y la aplicación de las recetas austericidas

como en el caso de grecia llevaron a la subida desorbitada de los precios que acompañada de la bajada de los salarios hizo que el pueblo venezolano no pudiera acceder a los pocos productos básicos

y la represión a sangre y fuego de este estallido social que dejó un saldo mínimo de alrededor de trescientos muertos según datos oficiales

cientos de desaparecidos y miles de heridos en aquella época para acabar con las protestas que generaron las medidas de austeridad el gobierno llegó a suspender las garantías constitucionales

comió comida de perro ya que era lo único que podían permitirse comprar la comida se llamaba

españoles no hablaban ni de régimen político ni de opositores ni de nada ni tan siquiera defendían la vida de los posiblemente miles

pero sigamos hablando de esa venezuela bucólica que ustedes veneran

leo un titular ametrallados cuatro autobuses universitarios por la guardia nacional en este contexto de democracia libertad y libre comercio bajo el paraguas del gran libertador yanqui

exigían saber al gobierno dónde tenían enterrados a sus hijos e hijas lo mismo que sucede hoy por ejemplo en méxico frente a estos crímenes que nunca fueron investigados y que por supuesto ustedes nunca pidieron sanción alguna

que durante los altercados más recientes siendo cierto que algunas de esas víctimas se han producido entre los manifestantes un rápido recuento de las víctimas mortales destapa a una oposición que con sus acciones se ha cobrado la vida de un gran número de ciudadanos

víctimas entre los manifestantes opositores trece tres de las víctimas serían achacables a los miembros de los cuerpos de seguridad del estado que en estos momentos se encuentran suspendidos

a disparos efectuados por civiles armados víctimas causadas por los elementos de la oposición veinticinco

el resto fallece a causa de disparos efectuados por manifestantes opositores

se sucedieron las ilegalizaciones encarcelaciones

unida y puede dar su opinión en la calle en los medios venezolanos y en los medios extranjeros pero teniendo en cuenta que algunos de ustedes apoyan la encarcelación de personas por el mero hecho de hacer política en el estado español no puede pedirles que lo entiendan

estaba en vigor el pacto de punto fijo que permitía mediante el fraude electoral

de las clases empobrecidas no estaban censadas por lo que no podían ejercer su derecho al voto la cuarto república tampoco se caracterizó por el respeto a la libertad de prensa pese a que a la mayoría de los medios privados del país estaban en manos de unas pocas familias acaudaladas de las clases elitistas a acciones al gobierno los atriles por ejemplo

deteniendo a periodistas que pretendían dar a conocer la situación que se vivía en el país eran cotidianos los asesinatos las coacciones contra periodistas los mismos que hoy en día

y otros países sudamericanos con los que ustedes mantienen relaciones preferentes y es que

como se puede observar de las diez cadenas de televisión más vistas e importantes del país solo cuatro son de dominio público mientras que seis lo son de origen privado en lo que se refiere a la prensa escrita la proporción es menos igualitaria de los seis periódicos más importantes solo uno es estatal

las radios privadas suman el noventa y siete coma dos del total de las radios más influyentes e importantes ustedes que hablan de pluralismo son los mismos que no critican que en el estado español el conjunto de los medios de comunicación

sin embargo el problema lo tiene venezuela y no los encausados por egin o egunkaria

la participación tanto del gobierno español de aznar como de determinadas empresas trasnacionales españolas

últimamente asistimos a golpes de estados blandos en diversos países del mundo golpes de estados con los que se intenta desestabilizar a gobiernos democráticos con el fin de imponer

a ustedes puede que no les guste ni maduro ni chávez ni correa ni morales ni pepe múgica a pesar de fotos oportunistas ni muchos otros aun así deberían respetar

de los diferentes pueblos aunque no les guste porque ganan elecciones y eso es lo que les duele deberían respetarlas ya sean venezuela

y presionar en favor de los intereses de los poderosos y de las élites económicas quizás lo que les duele de verdad es que las desigualdades en venezuela se han reducido lo dicen los datos macro y microeconómicos de organismos internacionales quizás no les guste que los empobrecidos sean menos pobres gracias a un gobierno

y de las empresas quizá en el fondo lo que sucede es que ustedes priorizan otras cuestiones como el poder